por los ratios defectivos policiales vamos a hacer números hace cinco años

tres mil quinientos policías municipales tres mil guardias civiles mil quinientos policías nacionales un total de

a día de hoy contamos con siete mil ertzainas tres mil quinientos policías municipales

y mil trescientos ochenta y uno policías nacionales en total

un decremento notable en lo que nos interesa en este punto se ha producido un descenso

y del nueve coma seis por ciento de policía nacional lo consideramos un buen dato una tendencia que consideramos positiva y que creemos además se debe de profundizar

hace cinco años teníamos siete coma tres policías por mil habitantes en esta población

habitantes y hoy en territorio vasco tenemos seis coma cinco policías

interesante mejoramos pero consideramos que poco comparando con esos ratios europeos que nos aconsejan dos policías

todavía estamos ciertamente muy lejos en bélgica la proporción es de tres coma siete policías por mil habitantes en alemania del dos coma nueve en irlanda del dos coma seis y finlandia o suecia llegan incluso a uno coma cuatro policías por mil habitantes

consejo de ratio europeo de dos policías por mil habitantes deberíamos de estar aquí con nuestra población en torno a los cuatro mil trescientos treinta y dos efectivos policiales no es un planteamiento

simplemente hago números establezco cuál debería de ser la tendencia adecuada hacia dónde deberíamos mirar y no precisamente como parece algunas declaraciones nos lleva a la dirección

opuesta tercero porque ante estos ratios hay que decidir qué es prescindible porque lo pagamos nosotros y nosotras de andrés

eurenak ez diren jardunak egiten eurenak ez diren eskumenak betetzen cinco por su falta de encaje estatutario y por lo tanto de encaje normativo ayer supimos por una información dada por la consejería de seguridad que las fuerzas de seguridad del estado han puesto en el último año mil setecientos cincuenta y cuatro controles de carretera son exactamente mil setecientos cincuenta y cuatro controles de carretera más de los que tienen competencia

cierto que son menos que otros años nuevamente una tasa decreciente pero nuestra aspiración es que cuanto antes estos controles lleguen al número de

estando de acuerdo con ello consideramos que el estatuto en materia de seguridad está a términos iguales incumplido y obsoleto incumplido por esta invasión que expresó la propia consejera y obsoleto porque creo que es mayoritaria la demanda de que incluso estas competencias residuales que recoge el estatuto para las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado

ejercidas por policías vascas porque creo que es amplia la aspiración de que nosotros y nosotras podamos organizar podemos reorganizar

en base a nuestros recursos en base a nuestras necesidades en base a nuestro presupuesto en base a las tasas objetivas de criminalidad que tenemos

en base en definitiva a lo que desde eh bildu consideramos

nos corresponde como un pueblo que aspira a la soberanía también en el ámbito de la seguridad sexto y último por reivindicación histórica estamos celebrando el ochenta aniversario de hechos trascendentales entre ellos también

decretó la disolución de la guardia civil y de la guardia de asalto y creó

de sustitución así viene titulada en el diccionario enciclopédico auñamendi

egindako urraketei buruz hitz egiten ha empezado su intervención hablando de las violaciones de los derechos humanos cometidas por los miembros

una vez más desde elkarrekin podemos sí que creemos que además del tema en sí que nos trae a este debate sobrevuela algo más que algo más de adecuar los diferentes ratios policiales a las necesidades

sino también sobrevuela una disputa por el relato una vez más ese relato

por qué porque creemos que es una forma también de plantear una vez más un debate sobre la responsabilidad desde esas fuerzas y cuerpos de seguridad en relación a

condenables pero también creemos que es una suerte de excusa para seguir haciendo discursos propios y de consumo propio y de cara

que nos aleja un poco y el acuerdo esta vez se ha ejecutado de otra manera de todas formas como tampoco quiero invertir mucho tiempo tratando esta cuestión y

la reducción y la adaptación de las fuerzas de seguridad

a ese tema y no entrar a esa batalla por el relato vamos a hablar efectivamente de cómo adecuar

y hacerlo en claves de la distribución de competencias entre las distintas administraciones y en función de las necesidades reales de la sociedad vasca en este sentido presentamos una enmienda a la totalidad a la propuesta que planteaba tres puntos que consistían de forma resumida en reclamar

de la poli nacional y de la guardia civil porque ya contamos con un cuerpo policial propio e integral que es el de la ertzaintza que esa reducción se enmarque en un plan

para ajustar los ratios policiales a las necesidades sociales reales

en el marco de la junta de seguridad en la que están representados tanto el gobierno vasco como el gobierno central y como comentábamos antes planteábamos cuestiones en términos de repartos competenciales de racionalizar la dimensión de los cuerpos policiales y de hacerlo con forme a la ley y en los espacios institucionales

esta cuestión hacer planteamientos en estas claves nos permite llegar a acuerdos en este caso hemos podido y sabido llegar a un acuerdo mayoritario con el pnv y con el partido socialista en el cual si bien es cierto

no renunciamos más adelante a seguir solicitando un plan que debería de ser aprobado por este parlamento para la adecuación y reducción de esos cuerpos de seguridad y transferencia competencial que se debe de dar en esos espacios

sigue la misma lógica de la enmienda que presentamos hablar de competencias hablar de racionalizar la dimensión de estos cuerpos policiales

o el acuerdo del trece de marzo de mil novecientos ochenta y nueve sobre la delimitación de los servicios entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y la policía autónoma vasca en la cav dentro del acuerdo al que hemos llegado con pnv y pse se ha introducido otro aspecto relevante que sí que consideramos importante

frente al cuestionamiento permanente que desde el gobierno central se hace tanto de sus competencias

que nosotros aspiramos a un momento a que sea un amplio planteamiento de policía integrada o su participación

y más aun en el contexto actual sin duda defendemos todos estos aspectos sencillamente para concluir quiero poner en valor

las fuerzas políticas de esta cámara de llegar a acuerdos en cuestiones sensibles incluso complejas como esta y en esta cuestión

a la memoria y la convivencia en este país sin renunciar a nuestro papel de exigencia democrática y social

presidenta señorías señor arzuaga yo creo que lo mejor de su iniciativa

de verdad han estado al lado de la causa del dolor y de la amargura hoy que se sienten

las consecuencias de ese dolor y esa amargura con la presencia de un número de policías de guardias civiles y de policía en general sensiblemente superior a la que realmente necesitaría este país si hubiera vivido toda la etapa democrática defendiendo y respetando los derechos humanos y ustedes

efectivamente en estos momentos no tendríamos esas ratios de policía por población

que han dado cobijo al problema es razonable que ustedes pidan ahora que la policía sea adecuada

y también a las funciones que tienen efectivamente en euskadi ha habido mucho dolor y mucha amargura

lo han creado los terroristas de eta esos terroristas que usted todavía no condena

es una completa chapuza porque se inventa un país tratando de confundir lo político con lo cultural porque se inventa una población se inventa también unos números de policía y además

en ese conflicto al que usted alude que no existe porque jamás ha existido un conflicto ha existido el terrorismo de eta

que matar estuvo mal y que no hubo ninguna justificación para hacerlo pues lógicamente le da una cierta poesía

esconder la actuación de unos terroristas en lo que han hecho que ha sido terrorismo

y su parte dispositiva es todavía mucho más porque cuando uno arranca mal cuando uno arranca con la irrealidad

pues empieza diciendo en el primer punto de su disposición que se vaya la policía la guardia civil y el ejército pero no dice ni tan siquiera de dónde y además incluye también al ejercito aunque luego aquí no ha hecho ninguna mención

que se haga solamente desde euskadi y finalmente dice en un gesto supongo que de apertura hacia quienes tienen otras competencias en última instancia que se vaya

por la adecuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado

por un gobierno de españa por un ministerio del interior y por un gobierno vasco por una

de seguridad por lo tanto es el término que ambas partes consideraron en su día razonable para tratar a través de la junta de seguridad de ir dándole cauce a esa expresión nosotros estamos de acuerdo con la adecuación de la policía y estamos de acuerdo porque efectivamente hay otros tiempos

porque hay cobertura legal porque hay una policía que puede asumir un comportamiento de policía integral porque

a ellas y porque es razonable que el número de policías que los cuerpos y fuerzas de seguridad que haya en el país vasco en su conjunto estén en una proporción razonable a lo que pueden estar en otros lugares que sí han vivido en libertad y en democracia que sí han vivido en defensa y respeto de los derechos

en la medida en que aquí se avanza efectivamente hay que tratar de acercarse y de homologarse a ello pero eso hay que hacerlo con rigor hay que hacerlo bien hecho

aunque yo también veo que usted ha bajado después el tono y ha ido tratando de suavizar y ha ido tratando de encontrar algún lugar común

la propuesta de transacción con la que se ha trabajado posteriormente a mí me parece bien que pueda haber un planteamiento más razonable y más mesurado aunque lo ha empezado francamente mal pero me parece bien que pueda haber

ahora yo no sé si hay aquí un conflicto de relatos pero desde luego no se va a imponer el relato falso y el relato de la mentira de lo que

si usted todavía no tiene el valor ni la convicción democrática suficiente para condenar el terrorismo de eta ese es su problema yo sí lo tengo y para condenar todas las actitudes absolutamente violentas y en ese escenario es en el que han estado las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y las propias las vascas y por eso hay mucho guardias civiles asesinados por eso hay muchos policías nacionales asesinados y por eso hay también ertzaina asesinada a la que

también la quieren desprestigiar la quieren perseguir y la quieren colocar no al servicio de la seguridad de la ciudadanía vasca sino más bien al servicio de la vulneración

tendrán que hacer el tránsito lo tendrán que hacer alguna vez nosotros trataremos de poner desde la razón y desde el rigor las bases de que se puedan hacer

pero desde luego que el procedimiento será adecuación será en una junta de seguridad será con el ministerio del interior y con la consejería de seguridad será

codo con codo unos y otros efectivamente hay que evitar que a estas alturas de la vida una parte de esa actividad de funcionarios de las administraciones públicas de territorio común y vascas estén en un campo de duplicidades

en relación con el desarrollo competencial o no puedan acceder a competencias que sí están establecidas en el estatuto de gernika por supuesto que nosotros reivindicamos y reclamamos lo estamos haciendo

y estamos reclamando que además se revise todo lo que hemos

como se hace en las sociedades democráticas se hace civilizadamente no se hará nunca con el que se vayan se hará civilizadamente se hará institucionalmente se hará con el rigor y con la razón política y esto es lo que a usted le falta por todos los lados

que se ha hecho con podemos partiendo de una enmienda que teníamos el partido nacionalista vasco y nosotros y partiendo de una enmienda que también tenía podemos creo que la aportación fundamental es que además se le pone una temporalidad a ese trabajo efectivamente está bien que el parlamento le diga a la junta de seguridad que se reúna y que en un tiempo razonable de un año traten de ir avanzando en criterios para la adecuación

sus competencias y a lo que es su legítima defensa

aquí hay una actividad que depende del gobierno de españa aquí hay competencias que dependen del gobierno de españa aquí hay seguridad que depende del gobierno de españa y es

que en una serie de competencias que son del estado haya una seguridad del estado

la policía autónoma la ertzaintza tiene ya motivos

para hacerse más mayor para tener más competencias para que las que tiene se respeten

reponer las plantillas en la medida en que son necesarias en el objetivo que en su día fue consensuado de cuál es la cifra de ertzainas que tiene que haber en el país vasco yo apelaría

esa razón y ese rigor fuera también atendida por el gobierno de españa fuera también atendida por el partido popular no vaya a ser que a veces

resulta que en veinticuatro horas empieza a ser posible porque en algún sitio para tomar una decisión política hace falta los votos del partido nacionalista vasco

y se arreglan muchos recursos se arreglan muchos enconamientos y se demuestra una vez más a veces de los argumentos para estar sosteniendo eso en el dique seco por lo tanto aquí todos tenemos que hacer alguna cosa todos tenemos que ponernos manos a la obra todos los grupos somos necesarios para hacer este tránsito en el que

país se han perdido tantas vidas se ha asesinado tanto

y por eso ha hecho falta que estuviera reforzada esa seguridad en estos momentos afortunadamente y gracias a la resistencia de los demócratas

y ese tiempo también se tiene que manifestar en la política de seguridad muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

legalidad una cuestión de respeto a las normas a los acuerdos y al ordenamiento jurídico

de defensa del marco competencial de autogobierno pactado y refrendado por la ciudadanía vasca

tratan en definitiva de evitar cumplir la ley la situación actual no tiene justificación la ertzaintza está desplegada y ha asumido la práctica totalidad de las funciones policiales no tiene justificación que en estas circunstancias el número de efectivos de la guardia civil y policía nacional

menos justificación si cabe cuando la actividad de eta ha desaparecido esta era una de las primeras actividades o competencias que tenía este cuerpo policial

el gobierno español pretende hacer como que no ha pasado nada pero sí ha pasado y mucho el gobierno español no quiere atender esta nueva realidad y se niega a cumplir la ley el gobierno español no escucha los posicionamientos de las instituciones vascas no responde a las peticiones de la consejera de seguridad no convoca la junta de seguridad

toda la anterior legislatura sin convocar la junta una sola vez no hay diálogo no hay respeto no quieren sentarse a negociar no responden a los emplazamientos del gobierno vasco este distanciamiento deliberado es grave pero es más grave la estrategia de fondo porque el gobierno español sigue poniendo trabas al desarrollo pleno de la ertzaintza es más grave porque el gobierno español

sigue llevando a los tribunales a las últimas promociones hoy denunciamos nuevamente

contraria al autogobierno vasco contraria a las instituciones vascas contraria por tanto a la ley que dicen defender la dotación de ocho mil agentes es un pacto es un pacto

es la dotación que la junta de seguridad acordó para garantizar la seguridad en euskadi en este parlamento defendemos y respetamos el estatuto de autonomía defendamos defendemos y respetamos a la ertzaintza como policía integral

el gobierno español incumple el pacto incumple su palabra incumple la ley y se permite cuestionar un acuerdo suscrito para garantizar la seguridad no cumple la palabra dada el ministerio de interior español se ha convertido se ha declarado insumiso a los hechos me remito según los datos aportados por el ministerio de interior y el departamento de seguridad del gobierno vasco en euskadi tenemos

cincuenta y cuatro de los cuales de la veinticinco promoción están ahora en prácticas y pendientes de una resolución judicial

de las diferentes policías locales tenemos el ratio de agentes por persona más elevado de europa en euskadi tenemos casi siete agentes por cada mil habitantes el doble de la proporción correspondiente a los estados de la unión europea con el dos coma nueve alemania el tres coma nueve francia el dos coma seis en irlanda

era clara y lógica en un escenario sin eta con la delincuencia descendiendo año a año el ratio de agentes se debería adecuar a la media europea

a la vista de estos datos a la vista de la nueva realidad es obligado cumplir la previsión legal y

y funciones de las fuerzas de seguridad en euskadi no hay razón ya que justifique el mantenimiento del desproporcionado número de efectivos que hay en la actualidad el terrorismo de eta afortunadamente es parte de nuestro pasado las necesidades de seguridad que percibe y reclama la sociedad vasca en otros parámetros y los partidos firmantes de la enmienda transaccional compartimos

es una policía integral y es lo que queremos defender con nuestra enmienda actuemos pues en consecuencia dejemos de cuestionar por la vía del recurso

racionales y consensuados acordes a la nueva realidad que vivimos es incomprensible la negativa del gobierno español a convocar la junta de seguridad después de casi cinco años demandamos un cambio radical de actitud demandamos que el gobierno español retome la senda del diálogo institucional que nunca debería haber abandonado

buenas tardes a todos gracias señora presidenta el otro día

que traía el señor sémper sobre medidas que evitasen que nuestros jóvenes

los homenajes a terroristas se nos culpaba al partido popular de reiterar estos debates en esta cámara verdad y además pareciera en ese momento que el problema no es que esos actos que se vivieron en algunos institutos guipuzcoanos

en la política de deslegitimización del terrorismo no el problema parecía

de debates a esta cámara qué era eso de reiterar ese tipo de debates sobre el terrorismo en esa cámara pues bien hay otros que traen asuntos a esta cámara como el señor arzuaga que la convierten en el auténtico

porque de verdad cuántas veces hemos hablado de el repliegue que ahora me referiré a lo que entienden algunos

de la guardia civil de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y ahora lo que se solicita es la retirada total de la policía nacional

el ejército español y supongo que todos los guardas de seguridad que no tengan determinado

que la planificación de la retirada se elaborará por el departamento de seguridad y se debatirá en este parlamento eso sí al ministerio de interior a través de la junta de seguridad se le deja si acaso implementar esta retirada

salvo la primera parte vergonzante a la que luego me referiré se plantea desde un punto de vista económico y desde un punto de vista político desde un punto de vista económico se nos quiere hacer ver el ingente gasto que según los proponentes supone mantener las fuerzas de seguridad en euskadi nada se dice del ingente gasto para esta tierra

el sufrimiento y gasto no solo económico sino gasto en personal en personas y sufrimiento pero bien desde el punto de vista político

residuales por cierto que eso es verdad que no es exclusiva suya señor arzuaga también la propia consejera lo ha dicho

lo he dicho en otras ocasiones y lo reitero la policía nacional y la guardia civil están aquí por derecho propio porque tienen competencias

ya lo hemos oído aquí la constitución en su artículo ciento cuatro la ley orgánica dos barra ochenta y seis de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado artículos uno y tres estatuto de gernika

y por último el acuerdo de trece de marzo de mil novecientos ochenta y nueve sobre delimitación de servicios entre fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y policía autónoma vasca jurídicamente por tanto

la labor que estos cuerpos realizan en euskadi está totalmente cubierta tienen competencias entre otras cuestiones en el control de fronteras en la intervención de armas y explosivos

en investigaciones supracomunitarias en la lucha contra el terrorismo en expedición de documentos de identidad pasaportes etcétera hay que señalar

han visto reducidos sus efectivos en nuestra comunidad al igual que en el resto de españa pero no nos engañemos la petición va mucho más allá del reajuste como algunos le han llamado una petición como decía antes que se une

su primera comparecencia igual que en la legislatura anterior la dedicó para hacer un apartado un capítulo especial sobre el repliegue

total porque solo de esa manera se puede entender cuando habló de policía exclusiva

sobre si era eso lo que contenía el acuerdo con el partido socialista de euskadi

no hacer más evidente que el papel de convidado de piedra que en muchas ocasiones tienen ustedes señores socialistas trataba de ofrecernos una clase de etimología y dándonos una versión de lo que debe entenderse por policía y haciéndola sinónima de integral pero yo les digo lo que es exclusiva ahora según el diccionario exclusivo único solo excluyendo

y sobra la guardia civil es más en una entrevista en un medio de comunicación que no tiene desperdicio también se señaló que las competencias de la policía y de la guardia civil son residuales

controlar casi treinta y uno millónes de explosivos en el último año es residual intervenir y detener casi una decena de grupos de delincuencia organizada en operaciones

en delitos de tráfico internacional de cocaína o speed es residual

es residual la lucha contra el terrorismo yihadista la detención que se realizó ayer es residual o no

no hay ninguna estructura organizada que haga sospechosa de que se va a producir una actuación inminente declaraciones que han sido censuradas por los propios agentes pero volviendo a si son residuales o no

el carácter de sus competencias ni en un tema económico

el origen hay que buscarlo en esa reivindicación nacionalista de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado deben abandonar euskadi en el alde hemendik de siempre esa es la única justificación tanto

de la justificación que hay hoy aquí porque es verdad que eta

señor iturrate que no hacían representaciones teatrales no sus asesinatos es lo que han cesado hace un tiempo pero es verdad que ha cesado la actividad armada

por la existencia de eta pero es que además ha resultado vergonzoso esa primera razón que ha dado usted

para pedir que se vayan agravios los que ha sufrido la guardia civil en forma de asesinatos de coacciones y de amenazas que ustedes

cualquiera que leyera la justificación de esta proposición

no podría formarse una idea de lo que ha pasado en euskadi en otras ocasiones usted ha hablado de la actividad

como le he dicho en otras ocasiones son maestros de la manipulación del lenguaje y con ello lo que pretenden es rebajar las acciones de eta en el texto

y que ello ha multiplicado la presencia de las fuerzas armadas españolas y francesas en este país no era un conflicto armado señoras y señores de bildu

lo que ha hecho eta en este país tiene un nombre muy claro y se lo voy a decir yo era

terrorismo que ustedes siguen sin condenar aquí no había dos bandos no existía el bando terrorista

libertador del pueblo vasco y el bando de la guardia civil la policía nacional y la ertzaintza contra

porque constreñía las libertades del pueblo vasco y de los que estaban luchando por ello como le digo aquí lo que había era una banda terrorista leyendo su iniciativa parece que no vivimos en el mismo sitio señor arzuaga dice usted bueno y se ha referido hoy también aquí

qué derechos constriñen serán los de los que delinquen

desde luego a mí que me paren en un control no me constriñe mis derechos y libertades porque se hacen por seguridad no por capricho pero usted

querido aquí mantener el repliegue no usted habla de retirada total

luego ya le daremos un poquito de la palabra al ministerio del interior pero más que nada para que ponga la guinda al pastel pero no mucho más y en referidos términos iba la enmienda de podemos aunque es verdad que ellos hablaban de disminución la enmienda del pnv y del pse en sus puntos uno y tres viene a decir adecuación señor prieto

el repliegue y adecuación por siguiendo la palabra

otros dicen que no que se tiene que decir aquí pero adecuación en cuántos

de euskadi para que consideren los socialistas que el número está

adecuado para el grupo popular se lo digo claramente funciones las que tienen reconocidas en las leyes número el suficiente para cumplir esas funciones el ministerio del interior que es el que tiene la responsabilidad y lo hablará en la junta de seguridad con los responsables autonómicos y desde aquí el reconocimiento y agradecimiento a la policía nacional a la guardia civil y a la ertzaintza por su trabajo

decía que empezaba con la más absoluta falta de rigor y terminaba en lo razonable orduan

ez daukala lekurik la señora llanos nos ha traído un listado de triunfos de

triunfos que ciertamente no son residuales pero son triunfos invasivos de competencias

otras policías de aquí tienen capacidad operativa para hacer y no lo entiendo porque si no es desde el punto de vista que busca perpetuarse cuando no se le necesita porque como

duplica actuaciones duplica competencias

más efectivos cuando la tendencia tiene que ser precisamente la contraria efectivos que no queremos y efectivos que vamos a tener que pagar nosotros y nosotras cierto que hay un

se empieza con la retirada repliegue disminución reducción adecuación y parece que es una especie de juego menguante

menos expectativa tiene menos exigencia o tienen menos ambición

dos tareas que tenemos que enfrentar la primera operativizar esa reclamación de retirada

y como he dicho primero para poderlos ajustar al ordenamiento actual

pero para pasar a un segundo ámbito que sería que esas competencias residuales culminaran con la asunción

vascas y de esa manera se podría llevar a cabo la retirada

para poder organizar nuestro propio sistema de seguridad y para ello consideraba que hacía falta un plan

no existe este plan la propia consejera me dijo en la comparecencia que hay que abordar dentro de la junta de seguridad la definición

competencias bajando a trazo fino nunca he evitado un discurso de trazo fino siempre he intentado ir a la raíz

dónde estaba la cuestión y dónde tendríamos que enfrentarnos a un plan que nos lleve

de este recorrido que es la retirada total de fuerzas y

y ese plan hoy no se ha traído podía ser un plan además que sea del parlamento que no sea solo del gobierno que tenga más amplitud que tenga más apoyo pero

genérico planteamiento de que dentro de un año vamos a revisar otra vez dónde nos encontramos y qué es lo que deberíamos de hacer hori zen eskatzen genuena

porque creo que la mayoría ha quedado dicho es evidente que hay un amplio consenso al respecto de una serie de cuestiones con

en euskadi la primera es que tenemos un ratio de presencia policial y que para nada está adecuado a la realidad social que vivimos en este momento la segunda es que existe un cuerpo policial integral que es la ertzaintza que puede cumplir con la mayoría de las competencias y que existe

y que además no se le respeta desde el gobierno central a la hora de desarrollarse por lo tanto yo me sumo

después de cinco años ponga en marcha la junta de seguridad

de manera ordenada y pactada una adecuación

en este contexto lo único que puede significar es reducción porque no tendría sentido de ninguna otra manera

en euskadi o que aumentar ese número como pedía de andrés lo cual desde nuestra

y que se avance cuanto antes en esa adecuación pactada y ordenada desde luego nosotros

siempre estaríamos de acuerdo porque cuanto más consenso tenga

alcanzar un plan en el espacio que probablemente conozca de la mejor manera la realidad social que existe en euskadi de cara a la adecuación de estos cuerpos pues mucho mejor luego trasladar eso

que evidentemente y que hoy ha quedado claro que es necesaria así que

por favor avancemos que se convoque cuanto antes esa junta de seguridad porque es una reclamación

yo creo que aquí todos podemos convenir que hay un número de policías en general excesivo a el nivel de población y por eso cada uno ha hecho

y que está reflejado en los textos que se han ido presentando ahora bien el ánimo la expresión la forma en que usted presenta este problema nosotros lo rechazamos de plano

y le sobran muchos elementos de seguridad a mí me faltan cuatrocientos trece policías nacionales y guardias civiles

trescientos asesinatos sin esclarecer me

armas que están escondidas y custodiadas todavía por terroristas esos son elementos

que estamos tratando y que nosotros no renunciamos a resolverlo correctamente atendiendo

dibujando una euskadi como si fuera nueva como si hubiera empezado con usted cuando usted ha tenido esta iniciativa

me habla de que igual algunos estamos muy en el pasado mientras usted mira al futuro

también en algunos medios de comunicación que algunos de ustedes les ponen en el pasado por el comportamiento y la política que están llevando en estos momentos

de interpretar y de plantear ese problema del que ustedes hablan en relación

probablemente quien está en el pasado todavía es usted

y buena parte de lo que ustedes representan no todo porque como hemos visto no hay esa misma opinión y esa misma posición por parte de todos los componentes de su coalición

señora llanos yo creo que

leer los textos porque usted me pregunta cuál es la policía que nosotros defendemos y usted ha hecho una definición de la policía que defiende

la que se pongan de acuerdo el ministerio de interior y

esa es la policía de acuerdo a las competencias de uno y otro de acuerdo a la defensa y a la seguridad que tienen que producir unos y otros dónde en la junta de seguridad está en manos de ellos no es este parlamento el que va a determinar cuánta policía nacional cuanta guardia civil cuanto ejército

o cuanta policía municipal necesita el país vasco sino que van a ser quienes tienen las competencias y va a ser además

que algunos han reclamado muchas veces de bilateralidad es decir entre ambos gobiernos por lo tanto en fin está a prueba de cualquier

el que leyendo simplemente la enmienda transaccional usted sepa cuál es la fórmula de esa adecuación porque

y toda la policía municipal toda la policía de seguridad que hay en euskadi en estos momentos es necesaria

pues mire le voy a dejar una reflexión a usted y a todos de acuerdo con algunos datos que se han dado aquí de acuerdo con los ratios que se han planteado por parte entre otros del señor iturrate que no hace nada más que coger ratios

de acuerdo con eso solamente se necesitarían en euskadi

fiscal superior de euskadi que sobre este tema preguntado en e te be uno

pero ha recordado que en estos momentos no hay terrorismo de eta y por suerte se necesitan menos policías en general en principio en euskadi vivimos seguros

disminuye no es alta en su momento era necesario más policía porque había terrorismo y más problemas en estos momentos afortunadamente las necesidades de seguridad son menores

que es una policía integral y añadía que euskadi es una parte de españa en estos momentos

por lo tanto ahí está la respuesta adecuación en cuántos en las competencias que le corresponden en las competencias exclusivas que le corresponden

vestir el incumplimiento de la ley el incumplimiento del estatuto cuántas vueltas a las palabras para vestir la falta de compromiso

integral como policía propia y eso es lo que hay que hacer adecuar cada uno a sus

respetar y permitir su acceso en tiempo real

y de la interpol su participación en los órganos de coordinación policiales europeos como una policía integral más en definitiva

la policía propia y la policía integral de este país porque en el listado que usted hacía señora llanos mezclaba churras con merinas interesadamente y mezclaba juntaba las competencias propias exclusivas que el estatuto define a las fuerzas y cuerpos de la seguridad del estado con las compartidas

cuando es una competencia que en primera instancia en este país porque la policía propia y la policía

y para eso hay que permitir que se desarrolle como policía integral que pueda participar como el resto de policías en todos los foros en los que hay que participar yo

el señor prieto daba el dato preguntaba usted adecuación en cuántos pues

estaríamos dando un ratio de tres coma seis agentes por mil habitantes bastante acercado o adecuado se acerca bastante

en la unión europea por lo tanto yo creo que lo que

la ley comprometerse con el cumplimiento del estatuto dejarse de vestir el santo que ya no admite más trajes y cumplir el estatuto y

gracias de nuevo señora presidenta bien

que vivimos encadenados al pasado miren si hay alguien en este país que vive todavía

sí que viven encadenados en el pasado no le parecían las operaciones residuales

en base a qué competencias las que tienen reconocidas ya le he dicho esos explosivos y esas son en operaciones supracomunitarias cuya competencia es de la guardia civil

que habla de desmilitarización efectivamente le sobra la guardia civil le sobra la policía nacional pero es que también le sobra la ertzaintza y yo lo quiero dejar claro hoy aquí al partido popular le gusta la guardia civil le gusta la policía nacional y le gusta la ertzaintza claro que le gusta

y donde se debe de decidir y donde se debe hablar efectivamente es en la junta de seguridad

no tanto para esto que también puede serlo para algunos pero para coordinación de fuerzas policiales lo que hay que hacer es no poner vetos a que se reúna

y si no no hay junta de seguridad eso es dialogar porque el diálogo como el camino se hace andando no basta con las proclamas

como una policía integral integral sí como les he dicho que no quiere decir sinónimo de exclusivo

el departamento de administración pública y justicia del gobierno vasco ante la resolución de la directora general de la academia vasca de policías y emergencias

establecía que el número de plazas convocadas debía respetar los criterios de la ley treinta y seis barra dos mil catorce

también para la guardia civil y la policía nacional es decir

cuando se convocó se tenía la advertencia no del gobierno de españa no del gobierno vasco y aun así se excedió en número a sabiendas creando inseguridad jurídica a sabiendas y qué debemos entender entonces aquí que por parte del departamento de administración pública y justicias del gobierno vasco se estaba cuestionando a la ertzaintza que a ese departamento con el señor erkoreka al frente

eso es lo que tenemos que entender porque ya les digo la advertencia y la provocación de la inseguridad jurídica viene por parte del gobierno vasco y no se trata de darle vueltas a las palabras señor iturrate para vueltas a las palabras las suyas

usted se sume a lo de que como eta

se tiene que ir desapareciendo pero el partido nacionalista vasco ha querido que se fuera siempre y aquí los

tenían la total y absoluta ausencia de los responsables institucionales del partido nacionalista vasco el alde hemendik

lo coreaban también ustedes pero lo que es más llamativo señor prieto es lo del partido socialista de euskadi lo suyo ya no sé si es adecuación o auténtica revelación que en el paso por lakua

la enmienda que ustedes aquí la que firmaban inicialmente y la que transaccional que después

en sus puntos uno y tres es prácticamente igual

llámele usted adecuación repliegue es lo mismo porque usted ha dicho que la adecuación viene a ser una disminución y un repliegue igual

sabe lo que hicieron ustedes entonces votar en contra y hoy la presentan pero es que la enmienda que ustedes presentaron aquí señor prieto

y qué han hecho ustedes votar en contra ya les digo auténtica revelación divina ya sé que usted no cree en dios pero vamos auténtica revelación divina

de verdad que ahora como le he dicho al señor iturrate ahora la campaña del alde hemendik es más suave verdad porque si no

en una verbena coreando el que se vayan se vayan se vayan y no sigo
porque me va a retirar la palabra la señora presidenta muchas gracias eskerrik asko llanos andrea eztabaida

megabatio orduko cien eurokoei kontua da elektrizitatearen

de esta iniciativa unos precios y unas subidas escandalosas que

las grandes compañías eléctricas de este país con una legislación

hecha al guante de sus intereses porque últimamente desde el gobierno

desde grandes medios de comunicación se ha hecho hincapié en la factura en lo difícil que es su lectura y no voy a negarlo porque así lo es y así lo hablamos hace quince días en este pleno pero para entender la subida de la electricidad en españa no necesitamos saber leer la factura ni aprender desde la escuela

ni de la parte liberalizada ni los peajes del sistema solo hay que saber como decía ahora que por mucho que algunas personas aquí o fuera les duela es que el libre mercado eléctrico es una

estafa no es más que un sistema oligárquico controlado por solo cinco empresas en este país con el objetivo de forrarse siempre y a costa de todos y de todas

ha explicado recientemente algunas de las razones que hemos citado ya que explicarían que cada

pagar este año más de cien euros más de factura decían

etcétera o lo que he citado ya de la energía nuclear en francia del parón que hacía que le tendríamos que exportar

que los países periféricos en concreto tengan que estar al servicio de los intereses de francia y de alemania y creo que no hace falta que recuerde quién gobierna en la comisión europea francia por ejemplo se aprovecha por tanto de la energía que exportamos de este país

los costes asociados que tienen es decir los consumidores del estado los vascos y las vascas también financiamos la energía barata

por estar en otros mercados súmese a esto que los consumidores han de pagar durante veinticinco años una deuda con las eléctricas de varios miles

de la historia hay dos patas fundamentales como saben en la fijación del precio

la suma de impuestos o del transporte de la electricidad tiene un papel fundamental pero además

o me gustaría decir clarificantes se paga a las compañías por su capacidad de producción es decir por sus instalaciones las pongan en marcha o produzcan o no y además se compensa a las grandes industrias por algo bautizado como el coste de ininterrumpibilidad

si en un momento de pico de consumo hubiese que cortar el cable algo que no ha producido atentos en más de una década

de prevención creo que algo malentendido un principio de prevención que además los partidos que han sustentado estas reformas en el sistema eléctrico no lo han tenido por ejemplo

europeo como vemos en esta parte regulada hay margen para actuar hay margen para bajar ese precio se lo dijimos también al gobierno

se podría no anticipar esos quinientos millónes de euros todos los años

y cuestionar esa supuesta legitimidad de la deuda que supuestamente tenemos con las eléctricas la segunda es la parte liberalizada la segunda parte de la fijación del precio

supuestamente ahora lo veremos por qué lo digo

de la oferta y la demanda y digo supuestamente porque yo me pregunto que si en condiciones meteorológicas favorables para la producción de energía y con una demanda o media

debería bajar con la misma intensidad el precio de que sube cuando no lo son pues me da a mí que no

eléctrico en alemania por ejemplo la mayor parte de la subasta de electricidad se produce o se realiza una vez al año y se puede planificar al menos en ese periodo de tiempo y no

estado y no solo es que sea diaria sino que funciona además aparte de diaria y de una forma especulativa de una forma torticera primero se establecen

de dónde lo van a llevar y tercero se produce el baile entre la oferta y la demanda hasta que convergen estas dos aquí se produce ese juego

y las que no pero el precio que se fija curiosamente es el de la energía más cara que entra al sistema y que lo hace además en el último momento

pero las eléctricas siempre se las alegran para ofertar ligeramente por debajo de la demanda prevista en lo que falta

que son las que acaban determinando el precio por supuesto que son las más caras podría pasarme también tiempo como iba haciendo

oligopolio eléctrico que lo que hace es que paguemos al final de mes ese precio abusivo tanto en las casas como también en nuestras empresas

la comisión nacional del mercado de la competencia que debería y que debería hacerlo y debería hacerlo mejor porque es verdad que se anunció en enero una investigación sobre el tema

invierno pero no nos parece suficiente y además desde el gobierno también se han puesto trabas en el congreso a la labor de control por eso reiteramos que esta comisión es la que tiene que hacer esa investigación y no una investigación ad hoc de lo que ha pasado

de la auditoria del sistema y además por si fuera poco también desde nuestro grupo parlamentario y en izquierda unida también de unidos podemos y de izquierda unida se ha presentado

una denuncia que ha sido admitida a trámite sobre lo que ha sucedido en este enero

por qué no auditar los precios de generación y de venta de electricidad por qué no auditar el conjunto del sistema y no solo cuestiones puntuales

algo que ver con ello y que tendrá algo que ver también con ello si miramos la nómina

desde nuestro grupo y en esa línea estamos y vamos a trabajar así lo hicimos

se hará en otras que se van a debatir próximamente de nuestro grupo en esta legislatura pensamos que es imprescindible un cambio de modelo energético un cambio basado en la transacción energética hacia las energías renovables sí y también basado en tratar a la energía y a otros suministros vitales como derechos y no como

de una fuerte intervención pública por eso en esta proposición y en la transacción que hemos acordado con eh bildu estamos pidiendo como camino

que nuestro parlamento inste al gobierno del estado a reformar el sistema tarifario pero además de una forma muy concreta que es instaurando unos precios máximos para las personas usuarias y también para las empresas

de criterios de renta para las personas usuarias unos precios que no superen en ningún caso tampoco la media de los precios que tenemos en europa y unos precios también que se ajusten a los costes reales y aquí la diferencia también con la enmienda

entre ese concepto de precios competitivos y la necesidad de hacer un debate para instaurar precios máximos a pagar por los usuarios y por las usuarias por tanto animo aunque sé que será en balde al resto de grupos

y de elkarrekin podemos porque además tuvimos un debate hace muy poquito

las facturas a las familias y a las personas que por su situación económica no lo podían hacer eso es una tarea que la tenemos que hacer mientras esto no cambie pero esta pnl y lo que dice esta pnl y esta transacción que hemos

y nuestro grupo va al camino de atajar el problema de raíz a reformar el sistema eléctrico a reformar el sistema tarifario para que sean unos precios justos para que sean unas facturas adecuadas también al consumo y que el oligopolio

vea recortados también sus derechos conquistados tras años y años de compra de votos en los parlamentos eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

datu garrantzitsuak baitaude y los primeros datos llamativos están en la propia planificación energética o en su falta el ejemplo ciento diez mil

casi el doble de la que existía en el año dos mil y supone muchísimo más de la potencia que se necesita el estado español está

de potencia eléctrica instalada por cabeza pero el consumo por cabeza no se encuentra ni entre los treinta primeros las inversiones que se han hecho son además de astronómicas sobredimensionadas y casi siempre innecesarias acumulando capacidad

se han hecho sobre unas expectativas alucinadas al abrigo de la burbuja especulativa de los años dos mil y sobre todo en un sistema de mercado o más bien de mercado condicionado o de mercado amañado y ahora la fiesta hay que pagarla y la fiesta no es cualquier cosa

de ciclo combinados de gas construidos en diez años y se paga por decisiones políticas a través de la tarifa de la luz y no habría por qué se paga a escote

ahalmen ordainketetan edo pagos por capacidad kontzeptuan

ley cincuenta y cuatro barra noventa y siete del sector eléctrico exposición de motivos no se considera necesario que el estado se reserve para sí

así se abandona la noción de servicio público repito

así que hoy también vengo con pancarta señora rojo o con eslogan proviene del

que es una gente increíble son comunidades rurales e indígenas desplazadas de sus tierras que hacen lo que pueden

ellos y ellas me enseñaron y me parece que podemos adoptarlo e incluso compartir el eslogan a ver qué le parece es muy corto y dice así

efectivamente este es un tema que nos preocupa y

también creo que el partido socialista ha presentado iniciativas en el congreso de los diputados que atañen a este tema en los que se puede ver reflejado la preocupación y qué medidas nosotros propondríamos para poder solventar esta preocupación generalizada en la sociedad en la sociedad vasca y la sociedad española en general

sobre todo la preocupación de esas familias que como decía el señor martínez

sobrevenidas otros por la crisis económica y es verdad que debemos ocuparnos de ello pero yo les querría hacer una pregunta no sé si vamos a utilizar este parlamento para

me parece bien porque mi partido tiene una posición clara en este y en otros temas

usted ha hablado de competencias que no le competen a este gobierno ha utilizado una intervención perfecta para el congreso de los diputados y para exigirle al gobierno del señor rajoy pero en fin la señora tapia en esto puede ir allí y plantear lo que el parlamento vasco opina pero la competencia no es nuestra y usted señor otero ha ido

a hablar de la soberanía usted cree que la soberanía en este tema solventaría los problemas de gestión sinceramente según está

según todo esto porque yo volvería a aquello que les planteaba en mi segundo turno aquel día en el que hablamos de pobreza energética es verdad que hay que hablar de la energía

pero vamos a hablar de verdad y le vuelvo a decir lo mismo quiere hablar de un nuevo modelo energético traiga el debate al parlamento vasco

tráigalo no para perder el tiempo y cuando llega la hora de firmar el acuerdo no porque realmente no queremos renunciar a nada en nuestro ideario política de la soberanía vamos a traer de verdad

nosotros y la inmensa mayoría de los ciudadanos vascos y del resto de españa hay opacidad en la factura eléctrica el ciudadano coge su factura y no sabe lo que paga

y en el noventa por ciento estoy de acuerdo pero es que estamos en el parlamento vasco

rellenar folios y folios pero ustedes saben que hoy por este no es el arreglo y por qué voy aquí

hay dos iniciativas planteadas en el congreso de los diputados que vienen muy

asunto y el partido socialista plantea cuatro medidas creo que son cuatro sí cuatro medidas referidas a este tema que creo que aquí compartimos excepto el partido popular supongo la mayoría uno un pacto por la energía ese pacto que yo estoy segura que aquí en euskadi es muy complicado

y no estábamos de acuerdo en nada señor otero

el diagnóstico es fantástico podemos hacer una tesis doctoral sobre cuál es la situación de la energía y de la preocupación ciudadana pero cuando un político se pone uno

no hay acuerdo y usted lo sabe por tanto pacto por la energía sí pero de verdad de verdad vamos a hablar de verdad

por qué porque ustedes generan frustración en el ciudadano porque con este debate les está diciendo y haciéndoles creer que depende lo que digan los parlamentarios vascos hoy aquí

para beneficiar en la calidad de vida del ciudadano y eso es mentira porque ustedes saben que eso no es así y yo comparto el objetivo de la iniciativa verdaderamente

podemos llevar a cabo punto dos auditoría independiente

podemos hacerlo aquí no reformar en profundidad el mercado eléctrico también lo han dicho estamos de acuerdo todos lo podía hacer la señora tapia

porque aunque queramos seguir profundizando en nuestro autogobierno que es la herramienta que nos hemos dotado porque creemos que somos capaces de llevar a este país donde está y mejorarlo a día de hoy no existe la competencia entonces yo hoy aquí puedo dedicarme diez minutos veinte y treinta y cinco

pero llenará hojas en las actas del parlamento vasco pero no servirá para nada y la política también es el ejercicio de lo posible

son una barbaridad han subido muchísimo como decía el señor martínez

más de cien euros al año es verdad y eso hay que tratarlo

y luego para seguir insistiendo en aquello que se propone en madrid que es lo que nos trae el señor martínez

en el marco de la reforma de la arquitectura institucional del organismo regulador y supervisor

aprobar de forma urgente las modificaciones legislativas necesarias claro que sí

por qué le digo esto porque el tema de la energía es un tema mucho más serio que venir aquí y decir no sé qué porque ustedes saben perfectamente que con el punto tres

le piden al gobierno vasco algo que no soluciona el problema porque ya me dirán ustedes con ese informe que proponen

porque yo quiero primero saber qué pagan los ciudadanos por lo que pagan qué reciben yo también estoy de acuerdo con que la energía debería ser un derecho yo y el partido socialista

queremos hablar de un nuevo modelo energético yo también pero seriamente del modelo energético

frontal contra el gobierno y contra los partidos que sustentan al gobierno pero a la hora de la verdad somos incapaces de definir ninguna línea

y así creo señor otero y señor martínez que no vamos a llegar a ningún sitio y sobre todo si el argumento que repiten y repiten son esas empresas enemigas que yo creo que tendrán en su casa carteles tachados de iberdrola porque madre mía

yo creo que no vendrán porque no sé es esos enemigos y luego peor

no esto luego esos beneficios intocables de los que ustedes hablan las ciclo combinado las térmicas el gas cuidado al señor lehendakari habla de euskadi gasística pero

cuál es la solución que ustedes ahora le incluyo a podemos dan para la situación energética de euskadi hoy solución pero díganoslo porque está muy bien criticarlo todo

enemigos oligopolios y no sé cuántas cosas más pero cuando llega la hora de concretar y ofrecerle al ciudadano vasco en forma de propuesta qué es lo que podemos aportar para la solución de eso no hay nada porque yo estoy de acuerdo criticar la política energética de hoy de el señor ministro el señor nadal

creo que hay que modificar el modelo energético que lleva este país no comparto la política energética que defiende el partido popular estoy de acuerdo pero cómo lo vamos a hacer y entonces vuelvo a lo mismo

a hacer política de trazo grueso entonces vamos a venir a concretar porque lo que

en el noventa y cinco por ciento de lo que ustedes demandan pero seamos incapaces de llegar a un acuerdo y el enemigo en este caso

porque es que hay una iniciativa también parlamentaria presentada por el partido socialista firmada por todos los partidos de la cámara

por tanto creo que debiéramos de unir las voces de los partidos políticos vascos en la crítica al gobierno de españa como pasó el otro día con garoña en el que mostramos más profunda condena a la política que están haciendo si es que así lo pensamos pero vengamos aquí a hacer política de verdad y no engañemos al ciudadano y no creemos falsas expectativas y no le digamos que está en manos de los políticos vascos cambiar el precio de la luz

es faltar a la verdad por tanto hace falta cambiar el modelo energético sí

hace falta sentarnos a hablar de esto sí hace falta mayor transparencia en la factura sí todo esto sí pero yo

consejos y estas cosas pero creo que en todo hay que buscar aliados y en esto también y esta iniciativa que es de un calado fundamental por lo que le afecta al ciudadano

convendría que uniéramos las fuerzas políticas que tenemos en pro del acuerdo y del pacto también en esto y no

para cogiendo debates que se hacen en madrid que están muy bien y que nos viene muy bien porque todos tenemos compañeros

pero que aquí no vale para nada porque mientras tenga la competencia de energía sea al cien por ciento competencia del gobierno de españa

mucha filosofía compartir objetivos pero poco podemos aportar eskerrik asko

impulsar un cambio legal para favorecer esta estructura de los mercados e impulsar medidas para la defensa de la competitividad del sistema productivo el coste de la energía

sino también un factor que genera malestar en la ciudadanía porque no se entiende ni el recibo ni las tarifas que se están aplicando creemos

que la situación pasa por revisar el sistema por ser transparentes con los ciudadanos y ciudadanas y darles de una vez por todas una solución eficaz creemos que es necesaria una revisión del sistema de las tarifas e incluso como ustedes una auditoria de costes es decir necesitamos cuanto antes un diagnóstico para buscar soluciones y para esto

en una política basada sobre todo en el déficit de tarifa y sin ninguna coordinación

que el gobierno diga que no tiene nada que hacer que dependemos de la lluvia y de que haya un mercado mayorista sometido a la volatilidad del viento y que si las circunstancias climatológicas acompañan la cosa irá a mejor y si no

creemos que el gobierno el del estado tiene mucho que decir en el ámbito de los costes del sistema de todos los peajes y también en materia impositiva como aquí se ha dicho

en más del sesenta y cinco por ciento de lo que supone la factura eléctrica parece que hay un mercado mayorista sometido a la volatilidad de las tecnologías y del momento pero no el gobierno también tiene una influencia decisiva con su intervención o no intervención en los costes y lo que se necesita

y no de hombre del tiempo o de comentarista de lo que está ocurriendo resulta terrible oír del máximo responsable de la política energética y tarifaria

sin que de manera inmediata explique qué va a hacer para remediar esta situación el estado español es el único país de su entorno en el que actualmente

la potestad de fijar los precios de la electricidad en lugar del organismo regulador tal y como se le viene incluso solicitando por parte de la propia unión europea pero como décimos mientras esto siga así

sino aportar soluciones hoy más que nunca un sistema equilibrado entre lo que se paga y lo que se recibe necesitamos una profunda reforma del mercado eléctrico ya que hasta ahora ni ha protegido los intereses de los consumidores

ni proporciona un marco adecuado para impulsar las inversiones que la transición energética requiere la evolución de los precios de la electricidad

los precios siguen sin reflejar lo que cuesta realmente producir la energía y están sujetos a factores aleatorios relacionados con las condiciones meteorológicas como está ocurriendo en este momento

estamos de acuerdo con que es necesaria la reforma del sistema tarifario pero nosotros tenemos una propuesta concreta sacar de la factura aquellos conceptos que son ajenos al consumo energético y homologar los impuestos que pagamos por la electricidad con los europeos ya que a día de hoy estamos más de diez puntos por encima

en caso de ir a fórmulas de intervención en precio volveríamos a generar

y por ende para los usuarios otra cosa es intervenir por el lado del coste pero el gobierno del pp para solucionar un problema el de déficit de tarifa ha creado tres nuevos

los precios siguen sin reflejar lo que cuesta realmente producir la energía y tenemos los precios más altos de nuestro entorno tampoco sería mala idea

para ver si podemos tener precios más competitivos a la vez que garantizamos que se cubren todos los costes del sistema la generación el transporte la distribución y la comercialización

eta aldatu beharko litzatekela ere bai y no quiero desaprovechar la ocasión

y que por culpa de la regulación actual soporta unos costes eléctricos demasiado altos que conllevan

no es de recibo que mientras a través de una supuesta solidaridad interterritorial los consumidores que asumir sobrecargos por la producción de carbón por pagar a escote el déficit de las islas

o incluso un impuesto sobre un impuesto nuestras empresas tengan que asumir unos peajes desmedidos aquí también necesitamos un sistema de tarifas de acceso industriales equiparables a las del resto de europa y no discriminatorias porque a mayor competitividad mayor riqueza y a mayor riqueza mayor distribución de la misma y por lo tanto más bienestar para todos y para todas el señor martínez nos invita

no lo vamos a hacer ya lo siento y no es una cuestión de voluntad no vamos a votar a favor porque no estamos de acuerdo con lo que plantean

yo se la acepto en este momento pero ustedes no han tenido ninguna voluntad de llegar a un acuerdo con nosotros hasta hoy

por lo tanto en fin espero que a partir de ahora este tipo de cosas habiendo como hay creo miembros suficientes para poder llegar a acuerdos seamos capaces de trabajarlas de otra manera

que estamos debatiendo porque creo que no se ha entrado en ella en primer lugar me gustaría

hablemos del parlamento vasco por ejemplo y cuando se insta a un gobierno del estado de qué estado parís inglaterra grecia de qué país entonces

se ha firmado una enmienda de transacción que también se insta al gobierno del estado oiga la mesa sabrá dónde lo manda

desde luego que para el grupo popular es una preocupación el gran incremento que han tenido recientemente los precios de la energía

preocupación económica y de generación de empleo porque efectivamente social afecta a los consumidores afecta principalmente a aquellos

más baja y económica y de generación de empleo porque la energía es uno de los costes básicos en el sistema de producción y el aumento de esta energía

repercute también en la capacidad de generación de empleo por tanto coincidimos plenamente en la necesidad de analizar las causas de esta subida y valorar qué margen de actuación tenemos como se ha hablado aquí ha habido en el mes de enero especialmente

un repunte un contexto de alto incremento de la demanda escasez de la oferta y encarecimiento de las materias primas energéticas

garantizan los servicios energéticos es decir las energías flexibles que están ahí para cuando no tenemos energías rígidas como son las renovables por ejemplo

que desde septiembre ahora ha subido un ciento setenta y dos por ciento como es el carbón

y qué ha pasado en españa en españa la demanda como ustedes saben ha sido muy elevada nuestra capacidad de producción de energía eólica ha sido

que fue fantástico en producción de este tipo de energías y la energía hidroeléctrica

estaban por debajo del cincuenta por ciento de lo habitual y

muy económicas pero con nula capacidad de uso en este periodo y hablaban de los precios y la comparación de países de la luz

hemos tenido precios más bajos que bélgica suiza italia y francia

inventando nada porque he ido a las estadísticas y a los cuadros que marca eurostat y es lo que dicen los cuadros de eurostat no se está inventando el partido popular

y cuándo ocurría esto porque alemania y holanda utilizan mucho más carbón que gas

se dispara el precio por encima de los cien euros muy por encima del precio de españa aunque tenemos una situación

mix energético mismas circunstancias y mismo origen de abastecimiento de nuestras materias primas

tenemos mejor comportamiento que nuestros vecinos europeos que solo se mejoran cuando utilizan en lugar del gas pero ustedes saben que el carbón tiene un gran inconveniente es gran emisor de ce o dos eso complica el cumplimiento de los parámetros de los objetivos climáticos que todos nos hemos comprometido por otro lado la comisión europea en la reforma de los mercados que tiene ahora encima de la mesa fija su política en la eliminación del carbón como energía de respaldo por lo tanto cuando desaparezca el carbón como energía de respaldo

se mantendrán de los más bajos de europa visto el comportamiento en esta situación y hablaban del recibo y qué nos dice el recibo

pues en el recibo pagamos dos cosas por una parte la parte fija la disponibilidad de electricidad aquello que cuesta

energía esos costes fijos son las redes las torres los transformadores todas las instalaciones

las decisiones políticas que se incorporan a esta parte que una es como se ha dicho la solidaridad territorial es decir que

no es especialmente gravoso lo que es gravoso son las hipotecas adquiridas en otros años que no sé dónde estaban ustedes verdad pero es que aquí en ocho años subió un doscientos por ciento el precio de la luz

porque apoyaron los presupuestos y las decisiones del gobierno del señor zapatero también

de otras prebendas políticas necesarias

aquí también son responsables de esta situación porque esas hipotecas nos van a durar unos cuantos años y las tenemos que pagar entre todos y eso esta parte fija representa un sesenta por ciento del recibo de la luz un sesenta por ciento

con las reformas lo que hizo es parar

esta parte está congelada no meter más hipotecas

se ha incorporado para bajar esas hipotecas se ha incorporado crédito para bajar la hipoteca por lo tanto

la que depende del mercado mercado que si dependemos de las energías

que dependemos del tiempo pues claro o cómo funcionan los molinos cómo funcionan las placas

ni esto es cuestión de bromas no me parece serio que usted como representante del grupo que apoya al gobierno

con esa falta de respeto ante otros gobiernos vale eso no me parece de recibo

como les decía tenemos la parte variable una parte que depende del mercado que depende de

energía renovable suministrando o tenemos térmica que entonces sí que dependemos de los precios de los hidrocarburos lo que no tiene variabilidad es la nuclear pero

que es preocupante cómo han evolucionado claro que sí especialmente el mercado del gas y especialmente en españa y se han tomado decisiones sí se han tomado

parar o congelar la parte fija del recibo y por otra parte se han tomado decisiones especialmente con la comisión nacional de mercados y competencias que ya ha solicitado los informes detallados de todo lo que ha acontecido en todo este episodio en cuanto a garantías de competencia

medidas de acuerdo con la comisión para que se garantice una oferta de gas no abusiva y no y más competitiva por lo tanto sí se están tomando medidas

dicho esto yo creo que respondo perfectamente a la iniciativa que presentaba podemos y creo que el gobierno cumple perfectamente con lo que ustedes estaban pidiendo ahí y en algunos casos supera la iniciativa que ustedes presentaban el señor

esto es mucho más serio que todo eso esto es responder a unas necesidades porque los problemas se resuelven haciendo y tomando medidas no con eslogan

podemos mire ha dicho usted

palabras gruesas que ha utilizado esto no es cuestión de palabras gruesas esto es cuestión de tomar decisiones y creo que dar respuesta a los problemas de los ciudadanos y usted aquí no nos ha dado

podríamos estar en contra o a favor pero no ha dado ninguna respuesta y yo le pediría que sí señora rojo pacto por la energía claro está sobre la mesa

bueno si no se fían de los funcionarios del ministerio si no se fían de los organismos públicos

están porque los proporcionan los funcionarios y los organismos públicos reformar el mercado eléctrico podemos hablar claro que sí

por qué no creo que a eso no se va a cerrar nada y señor grajales

patosa sobre todo como representante como le decía del grupo político al que apoya el gobierno

el partido popular se ha cargado el sector de renovables no no ha puesto orden

juerga que había en el sector renovables no se ha cargado el sector

otra cosa es que hayamos cortado el chollo que algunas empresas se estaban montando a costa de todo nuestro dinero eso sí pero
no nos hemos cargado el sector de renovables amaitu mesedez nada más muchas gracias eskerrik asko

señora rojo yo pensaba que sabía que

que los temas son muchos y variados pero lo que no pensaba que como creo que la tercera vez

en esta sala y en la comisión sobre temas que supuestamente no son para debatir parlamento cosas que no son competencia nuestra yo me pregunto para qué entonces tenemos una comisión de asuntos exteriores por ejemplo que muchas de las cosas que se tratan en esa comisión

en mi opinión trabajo que hay que hacer en esa materia y en otras muchas

energía la auditoría independiente o la reforma del sistema eléctrico coincidamos ahí no le voy a decir que no pero también en el parlamento como decía al principio

que podamos hacer sin ningún tipo de problema

y ideológico porque evidentemente estoy de acuerdo con esos titulares pero estoy muy acostumbrado también a oír de parte del partido socialista cosas muy interesantes hasta que muchas veces llegamos al momento

o por ejemplo ayer mismo en bruselas y respecto al estudio que se propone dentro de la propuesta no de ley pactada con

hace quince días quedó fuera de la pnl de suministros vitales básicos la petición también

de los costes y de las competencias o de la legislación sobre

de distribución de energía hoy estamos también pidiendo

queremos tener los conocimientos y la opinión también del gobierno acerca de estos temas exactamente igual que lo hacemos ahora con

que hemos pactado y con gran parte de la intervención del señor grajales no puedo estar

más que de acuerdo pero sí que es verdad que en euskadi hay muchas cosas que podemos hacer y por ejemplo desde el año dos mil cinco al año dos mil quince por ejemplo

euskadi no ha evolucionado desde ese siete por ciento yo creo que aquí también podemos hacer cosas y señora lópez de ocariz

la verdad el gobierno del estado que es quien tiene la competencia

le tenemos que pedir lo que estamos pidiendo en esta proposición porque evidentemente que la energía es fuente de riqueza de empleo ni le cuento ya la energía renovable la riqueza que genera y los empleos de calidad que genera pero también hay que decir la actitud y las decisiones del gobierno del estado en esta materia en la última legislatura que lo que ha hecho es bajar

porque además me dice que no le ha quedado claro las soluciones que estamos planteando

en esta proposición pero es que tampoco has respondido a ninguna de las tres partes

ni la reforma del sistema tarifario ni por ejemplo qué opinión tiene sobre que tengamos que asumir el coste del proyecto castor entre todos y todas las ciudadanos y ciudadanas tampoco ha dicho nada sobre la reforma del iva ni tampoco ha dicho sobre los quinientos millónes de euros que adelantamos

del sistema que no ha pasado en los últimos diez años multipliquen hagan la suma de quinientos por diez y verá lo que estamos regalando año a año a todas estas eléctricas eskerrik asko eskerrik asko

señora lópez de ocariz yo creo que no ha dado casi ni una en todo lo que ha dicho y hay algunos datos que ha manipulado que me parece que merece especial atención

al gobierno zapatero yo le quiero recordar que el periodo que en el que más ha subido el precio de la luz es el periodo dos mil once dos mil dieciséis cuando ha subido un setenta y uno por ciento

y creo que estaban ustedes en el gobierno prácticamente todo ese tiempo y después tiene una confusión muy grande con el tema de la factura europea porque no es lo mismo

en los que habla de lo que vale el megavatio ahora en un país y otro estamos hablando de la factura que paga los ciudadanos de cada estado

para su bolsillo y hoy día el diferencial del estado ese estado es un treinta y cinco por ciento alrededor de un treinta y cinco por ciento superior superior y

que tenía que dar este tipo de explicaciones pero es como cuando uno le dice a un aficionado del athletic que a ver si va a ir a ver el partido a la catedral pues

no le responde a usted que si a la catedral de lyon o a la catedral de burgos

pues evidentemente usted me tiene que entender sin que yo le diga nada más porque para usted el estado evidentemente es ese uno grande y libre entonces estamos hablando del único estado

puede sentirse usted cómoda que no todos grajales jauna

no me da tiempo a todo porque usted habla rápido también dice muchas cosas acerca de las empresas amigas y enemigas y amigos de los enemigos y

para hablar de la corrupción de los sobornos de los casos de albania de letonia de méxico

pero evidentemente no me va a dar tiempo a tocar todo eso si eso repasamos en otro momento el dosier que es jugoso jugoso de verdad

con respecto a lo de las grandes empresas en un dictamen que en un proyecto de dictamen que hace para el comité de las regiones en la que señala señala

son los beneficios de los monopolios energéticos establecidos digo esto es esto es lo que debiera decir

que debiera decir esto y no lo que está diciendo usted que es como cada vez que tenemos un problema con los grandes monopolios ustedes nos acusan de no sé

a ver si me lo puede explicar y después para terminar en lo que queda

y que traigamos propuestas el partido socialista que yo sepa que se sepa aquí la propuesta energética o la más importante que ha traído por lo menos es la estrategia energética dos mil veinte cuando estaban ustedes en el gobierno dos mil once

y lo voy a leer la mejora tecnológica dirigida al desarrollo de los ya denominados yacimientos no convencionales

a diferencia con el convencional el gas no convencional no migra

por lo que para extraerlo es necesario estimular la formación que lo contiene creando permeabilidad artificial que permite fluir el gas

del gas no convencional y a estimular eso en mi pueblo y en el suyo se llama no solo eso no solo eso que es lo que ustedes empujaron no solo eso ustedes hablaban de la electrificación y que tenían como

en el periodo entre dos mil y dos mil quince para vehículos eléctricos si usted me puede

estaría agradecido creo que no llegan a cien muchas gracias eskerrik asko otero jauna euskal sozialistak rojo anderea

pase lo que pase unos hablan de zapatero que como ya le dije al señor barrio

y señor otero el tema del fracking no vale para todo uso y condición y desde luego menos para intentar interpelar a esta parlamentaria y menos que me lo diga usted cuando quiera hablamos del fracking todo lo que quiera y veremos quién fue más generoso

o mi partido cuando quiera porque lo que no se puede hacer es pretender hacer trampas y usted ha hecho de este debate la ceremonia de la confusión

enséñeme gráficos y si quiere un cartel de iberdrola tachado haga lo que quiera

iniciativa digo han traído porque aunque viene de elkarrekin podemos ustedes actúan como una especie de gobierno de coalición algo parecido al pnv y el partido socialista porque para llegar a un acuerdo

no han querido llegar a ningún acuerdo han pasado un texto y han dicho firmarían hombre pues no igual es que algunos llevamos mucho en política

pero eso no es negociar ni para una proposición no de ley ni para nada y ustedes aquí han traído una preocupación compartida que es lo alto que están los precios

para que les ayuden a pagar la factura y su intervención me parece una tomadura de pelo señor otero porque desde luego para llegar a la solución del problema la solución no es meterse con iberdrola que para mí no es enemigo que para usted sí

no es no es porque ustedes se lo vuelvo a decir mire lo que votan en madrid y mire lo que defienden en otras instituciones porque como le digo la iniciativa de la que yo le ha hablado

que hasta donde yo sé pertenece a esa bancada que hasta hace poco compartíamos compañía digo

en el tema de la energía tampoco no me parece a mí digo yo y luego continuando con esto

de que la pega que hemos tenido es hacer el estudio efectivamente para qué para qué quieren hacer un estudio para qué cuál es el objetivo de ese estudio

sí o no para qué ustedes lo único que quieren es buscar la confrontación porque para ustedes es más importante

que verdaderamente hacer política porque ustedes han buscado algo en lo que al gobierno le pueda parecer inoportuno o inadecuado para no llegar a un acuerdo

unamos las fuerzas políticas en beneficio del ciudadano al que le llega la factura que no puede pagar y dejemos a un lado

que no valen para nada y en este caso esto no vale para nada y ustedes lo saben y resulta que ustedes que han firmado hoy una enmienda transaccional los únicos han bajado a esta tribuna la segunda vez y no han hablado de su iniciativa

algo que el partido socialista por hablar del mío parece que ha dejado de hacer y resulta que los cuatro puntos auditoria reforma pacto de estado lo presentó la señora pilar lucio que hasta dónde sé es diputada socialista de extremadura y ustedes a favor estupendo

que estamos haciendo política para los vascos y que es verdad que muchas veces señor martínez puede hablar

todo confundir no y han traído algo

se implican para acabar hablando de cosas que nada tienen que ver

la política de lo posible tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad para solucionar problemas me quiere decir con lo que usted proponía si somos capaces de modificar el sistema que tenemos hoy para que el ciudadano tenga que pagar menos

pues no es que no es verdad y ustedes utilizan lo que preocupa al ciudadano para hablar de cosas que nada tienen que ver y no se trata

y que unos llevemos menos no diga que lleva oyendo no sé cuánto tiempo porque con todos mis respetos llevan poco tiempo todavía lo que les queda por oír

entonces no tengamos la piel tan suave porque aquí hay que oír y para no oír hay que proponer

y es lo que ustedes todavía no han aprendido pero yo confío y luego

yo no dudo de los funcionarios y cuando se ha dado una auditoría independiente no es porque se dude del cuerpo de funcionarios y usted lo sabe y con eso no se juega con eso no se juega porque también han sido funcionarios cuando ha gobernado un partido

me alegro mucho porque parece que ustedes van a votar a favor y luego una cosa que me ha hecho

que el partido popular lo que ha hecho es ordenar esto de las energías renovables

agresiva y entonces hablábamos de un ejemplo para que todo el mundo nos entienda en esto de hacer política para los ciudadanos

porque están todos los juguetes desperdigados el orden del partido popular es tiro los juguetes por la ventana

eso es lo que ustedes han hecho con las energías renovables han puesto primas las han ahogado y efectivamente la situación está como esta
por lo tanto me alegro que estén de acuerdo eskerrik asko con lo que propone el partido socialista

en la primera intervención porque porque nadie me ha entendido señor otero creo que en mi primera explicación quedaba bastante claro los porqués de porque no íbamos a apoyar su enmienda transaccional tanto por el fondo

respecto al punto primero de su propuesta sinceramente nos parece que el parlamento vasco insta a la comisión nacional del mercado de la competencia es un brindis al sol

han encontrado ya lo habrán dicho además es un órgano que como digo en este momento está incluso limitado en sus funciones del punto número dos estamos de acuerdo con los apartados cien y estamos de acuerdo con el apartado quinientos que se incluyen en la enmienda que nosotros hacíamos

un miedo feroz a las empresas sino porque realmente creemos que este es un mercado liberalizado y lo que necesita es una competencia real

yo no le voy a quitar a nadie que no estamos de acuerdo en cómo lo hacen las compañías pero ese es el treinta y cinco por ciento de la factura

si hubiese voluntad en el otro sesenta y cinco por lo tanto yo también les muestro mi buena voluntad y les solicito que se adhieran a nuestra enmienda que sí que es un mínimo común denominador en este caso

tampoco o no me ha oído bien o no me ha querido escuchar o aquí vale todo porque lo que yo no hago nunca

es ni faltar a las personas ni faltar a la verdad

este tema no da para bromas huelga decir que este aumento de los precios va a intensificar la reducción de la renta disponible

de las empresas con lo que eso supone de pérdida de competitividad por lo tanto bromas las justas yo simplemente he dicho

que es preocupante que el gobierno de turno en este caso el del partido popular

o de cronista de la realidad ya sé cómo se obtienen los números de la factura pero

que lo que es preocupante es que un gobierno nos narre cuáles son los problemas pero no ponga ni una medida para solucionar

están la de adoptar soluciones de forma rápida pero no necesariamente superficial y la de ser prudentes en las declaraciones y no generar alarma social y esto es precisamente lo que ha hecho el señor ministro esto sí que es una

y por terminar simplemente como usted ha dado unos datos

eurostat que ha retorcido convenientemente nos ha dado el precio de megavatio es decir usted de alguna manera ha dejado de lado

infla la factura por decisión del gobierno del partido popular en este momento yo también le voy a leer algo que dice textualmente eurostat y es

se concluye que de media las empresas españolas pagan el kilovatio eléctrico muy caro por encima del veintidós por ciento de la media europea y si se compara específicamente con países como francia o alemania

y un veintisiete por ciento más respectivamente y aquí más porque nos obligan a pagar peajes

pero insisto sin faltar a las personas y sin faltar a la

para ir a venezuela de visita o cosas así o sea que seguramente que los cogen con cariño y que lo van a usar

me hablaba del autoconsumo mire nosotros con el autoconsumo solo estamos en contra de que pueda aumentar el coste fijo

de quienes no hacen autoconsumo aquí el coste fijo lo pagamos entre todos porque todos vamos a tener

hay que pagarlos entre todos no los que no hacen autoconsumo van a pagar los costes fijos de los que hacen autoconsumo eso no estamos de acuerdo

del sistema tarifario me hablaba el señor grajales de los

mire y le digo al señor otero precio final de electricidad consumidores industriales estamos en la media de europa

están por debajo francia y finlandia y por encima italia grecia y alemania este es el dato es que es así

en el consumidor doméstico sí que tenemos por encima sí que estamos por encima eso es así pero es que tenemos un mix energético muy singular y nosotros españa tenemos un cuarenta y dos por ciento de energías sumando la renovable más la hidráulica energías rígidas que cuando se pueda acumular esa energía

cuando no funciona cuando no tenemos volumen de agua cuando no tenemos viento cuando no tenemos sol

que son caras claro como le digo qué hace alemania utiliza carbón

podemos hacerlo lo hacemos creo que es una apuesta

me ha hablado antes el portavoz del pnv de las industrias del país vasco y esa reclamación de los treinta kilovatios

el informe es negativo saben que se ha llegado al límite y querer ir más allá

iría al coste fijo a pagar entre todos oiga usted que va a hacer aumentar más el coste fijo claro la verdad es que no les terminamos de entender creo que es una reivindicación fuera de lugar ya en este momento pero yo me pregunto al grupo nacionalistas vascos yo tengo aquí un documento programa de gobierno dos mil doce dos mil dieciséis

treinta años ha venido desarrollando un modelo energético propio oiga me quiere decir dónde está el modelo energético propio treinta años cuando

en vizcaya el sesenta por ciento dónde está su modelo energético propio

ansiosa de verlo porque estamos hablando aquí de lo que hace madrid oiga ustedes treinta años

vamos a ser el top diez de las energías renovables somos los de la cola

en la cola y dónde está el modelo energético propio este que decían ustedes hace

dos mil doce señorías de verdad lo que le decía

en no hacer nada en criticar al gobierno de españa que es su afición es donde se desahogan ustedes

y solucionarlos y ustedes no ponen ninguna medida eskerrik asko